conocemos su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible para evolucionar hacia un nuevo modelo energético

en el horizonte del dos mil cincuenta de conformidad con los compromisos de la unión europea conocemos que la estrategia energética de euskadi dos mil treinta tiene la finalidad de aumentar la eficiencia energética de incrementar la utilización de energías renovables y profundizar

para una transición energética justa jakina da ere

está trabajando una nueva ley de transición energética y cambio climático dos mil treinta al tiempo que está impulsando una estrategia de energías renovables con la previsión de diversas actuaciones de distintas dimensiones y modos de gobernanza probablemente la más innovadora esté asociada a la iniciativa ekiola para la generación de energía fotovoltaica a través de cooperativas por ello señora tapia le traslado la siguiente pregunta

ekiola impulsada por el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente a través del ente vasco de la energía mila esker eskerrik asko grajales jauna

y nos da la impresión de que hay turbulencias tanto por las quejas constantes que debemos hacer hasta plasmarlo por escrito en el último plan como por las revisiones de los planes de gobierno que sugiere una cierta improvisación con una lista en agosto otra en diciembre ahora otra

se va a aprobar usted ha estado esta semana por madrid ya nos dirá si hablando de esto o no

desde diciembre se han producido avances en el conocimiento de cuestiones relacionadas con la gestión de los fondos

como sabe el mismo día de la aprobación de esta segunda versión de euskadi next pedí la comparecencia en esta cámara

el gobierno vasco es el responsable de diseñar las políticas públicas y de ejecutarlas y el parlamento ha de controlar la labor del gobierno entiendo que en el congreso de los diputados su grupo también habrá presentado una pregunta similar para poder codiseñar el plan nacional presentado a europa

en cualquier caso como sabe nuestro proyecto presupuestario incorpora un modelo gestor de suficiente transparencia garantía y flexibilidad informativa para que el aprovechamiento y maximización de los fondos

a las administraciones públicas la gestión completa de su planificación así como la gestión relacional y económica con el estado estamos trabajando intensamente con el gobierno del estado para ser capaces de absorber

espero contar con su apoyo y colaboración eskerrik asko

no hemos desistido y la semana pasada a propuesta nuestra esta cámara dio un impulso

mostrando que hay afán de acuerdo y que es posible entenderse

que esta disposición rompe el relato que llevan tiempo alimentando

eta euskadi nexten jasoa zegoen hemen y esto nos lleva a otra pregunta si los proyectos que están aquí dependen exclusivamente de las decisiones empresariales ajenas a este gobierno porque están en esta lista

en la que no tiene ningún control sobre las decisiones que se van a tomar

lo que ha pasado esta semana hace que este documento se halle obsoleto y la pregunta sería

y es más cuántos de estos proyectos no se van a hacer por no haber sabido sumar fuerzas ustedes ahora mismo tienen un dilema

si esto se hace de una manera compartida y asumida por todos pero para eso tienen que abrir el melón y eso tiene una consecuencia que el éxito sea grande o sea pequeño

pero entonces les tocaría asumir la responsabilidad de lo que no vaya bien y de momento las cosas no parece que vayan muy bien

los proyectos que están a la fuga behin eta berriro diogu

usted ha dicho fracasar no es una opción beraz alboratu alderdikeria

es un ejemplo de un proyecto recogido en el programa que recibe el apoyo de una gran mayoría de este parlamento vasco de lo que me alegro profundamente

mediante convocatorias en régimen de concurrencia competitiva como no puede ser de otra manera el estado ha puesto en marcha la famosa fórmula de las manifestaciones de interés

de recogida de proyectos los deriven a las administraciones que gestionaremos dichas convocatorias insisto deriven ustedes las propuestas a quienes tenemos la responsabilidad en este momento de ejecutar las políticas públicas

de la gravedad del momento en los próximos meses nos jugamos mucho y deseo que en euskadi seamos capaces de estarlo también el gran desafío que tenemos por delante

e inclusiva que contemple la perspectiva de género de manera

de forma continuada durante un tiempo superior a dos años salvo que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo

de la función social de la propiedad de la vivienda a través de diversas medidas

último informe sobre el uso de la vivienda en euskadi publicado por el departamento de planificación territorial vivienda y transporte que usted preside

un uno coma cuatro por ciento del parque de vivienda de euskadi

es fundamental para el diseño e implementación de programas de movilización de vivienda deshabitada como es por ejemplo el programa

recesión de dos mil veinte en el marco de la propia ley tres barra dos mil quince del dieciocho de junio de vivienda se contabilizan un total de cincuenta y tres mil quinientos treinta y tres viviendas deshabitadas en euskadi lo que supone un decremento de

un veintidós por ciento menos respecto al año dos mil diecisiete que fue el anterior estudio que se realizó sin duda alguna

en la política de vivienda en los últimos tiempos una desde luego es la propia ley de vivienda y otra sin duda alguna es el impulso a las políticas de alquiler y de movilización también de la vivienda deshabitada por el

de la anterior legislatura sin duda alguna hay que profundizar

las viviendas vacías incorporarlas al mercado y facilitar desde luego que aquellos demandantes de vivienda y especialmente los que son más vulnerables tengan la oportunidad

a un precio asequible impulsando también las políticas de alquiler social existe una previsible recesión ya a

el descenso en el precio de la vivienda lo que sin duda también puede ser una oportunidad para impulsar nuevas políticas o reforzar existentes por eso yo le formulo hoy aquí la siguiente pregunta qué tipo de medidas plantea su departamento para incentivar la movilización de vivienda vacía deshabitada en euskadi

como usted sabe el objetivo de las políticas de vivienda que desarrollamos en nuestro departamento es disponer de un parque de vivienda pública protegida suficiente para atender la demanda social en euskadi un objetivo que perseguimos impulsando la construcción de nuevas promociones públicas de alquiler y captando vivienda

al mercado del alquiler protegido la promoción de nueva vivienda

y una obligación para nuestro departamento pero necesita tiempo y esfuerzo continuado

y esto exige que tengamos que combinarla con herramientas que puedan dar respuesta a las necesidades de vivienda a corto plazo una de estas herramientas

la incorporación de vivienda al parque público de alquiler de forma inmediata al tiempo que dota a la vivienda vacía

el programa que dispone de un presupuesto de treinta y tres millónes de euros para dos mil veintiuno ha tenido en los últimos años un importante crecimiento

viviendas pero a pesar de ese esfuerzo sigue existiendo un volumen nada despreciable

trabajando en varios frentes uno es el decreto de vivienda deshabitada que esperamos aprobar en breve y que posibilitara la adopción de medidas tanto de fomento del alquiler como otras destinadas a penalizar

de forma injustificada con el pago de un canon anual o incluso el alquiler forzoso y la expropiación en casos extremos

a la coyuntura actual estamos ultimando una orden de medidas financieras que entre otras cuestiones contempla el aumento de la renta máxima que perciben las personas propietarias de viviendas que están en el programa bizigune una renta máxima que se incrementaría hasta seiscientos cincuenta euros mensuales

actuales un incremento cercano al diez por ciento que unido a las importantes garantías jurídicas y de mantenimiento que ofrece el programa ayudará

esta opción entre los propietarios la previsión es que esta nueva medida

y que obtengan una valoración económica acorde por parte de alokabide podrán llegar a percibir como he señalado hasta un máximo de seiscientos cincuenta euros también vamos a disponer que la medida pueda beneficiar a las viviendas que se han sumado al programa

o hayan renovado el contrato en este periodo y estén cobrando en estos momentos el máximo permitido de seiscientos euros siempre claro está

sea superior a esa cantidad en estos casos los propietarios no tendrán que realizar ningún trámite sino que será la propia sociedad pública quien se pondrá en contacto con ellos para comunicar la subida de la renta en el porcentaje que corresponda y su materialización

desde el uno de enero como ve distintas herramientas de gestión pero un mismo objetivo incrementar el parque público de vivienda

arau hauste oso larriengatik este organismo consideró que estas empresas estas veintidós

cárteles que manipularon licitaciones públicas durante al menos diez años y en esta trama se han visto implicadas varias empresas vascas y varios departamentos también del gobierno vasco

udaletxeak kontua da gainera de la que el análisis de los correos electrónicos que se han intercambiado entre los directivos de las firmas sancionadas y los gestores públicos se sugiere que contaban con información privilegiada

connivencia entre los directivos de los departamentos del gobierno vasco organismos autónomos y empresas públicas y las firmas que han sido sancionadas eskerrik asko

señora gorrotxategi usted decía relativamente bien la investigación de la comisión nacional de los mercados y la competencia en adelante

no se circunscribe a las administraciones públicas vascas son múltiples las administraciones y entidades públicas afectadas usted dice implicadas

ha considerado las consultoras como un cártel la resolución acredita la afectación a licitaciones públicas

no son las administraciones públicas las investigadas sino las empresas y en cuanto a las iniciativas adoptadas por el gobierno vasco hemos acreditado primero

fiscalizadas por los órganos de control interventor y por el tribunal vasco de cuentas públicas segundo ha realizado decenas de requerimientos de información a las distintas administraciones públicas licitadoras y con carácter general nuestra actuación en ningún momento ha sido puesta en cuestión por la cnmc tercero en la investigación de las licitaciones de los departamentos del gobierno vasco

primero le garantizo que no vamos a escatimar esfuerzos ni medios en colaborar con las investigaciones que al efecto se puedan poner en marcha

el gobierno va a poner a disposición del parlamento todas las contrataciones que se han llevado a cabo con las empresas afectadas y tercero el gobierno reitera su compromiso pleno con las buenas prácticas
en la contratación pública y con la aplicación estricta de la legalidad vigente eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

no desaparece la preocupación hay motivos de preocupación muy grave además

por una parte porque estas prácticas han supuesto sobrecostes muy importantes para la hacienda vasca y esto hay que tenerlo en cuenta en segundo lugar porque estos

por ejemplo el plan estratégico de viviendas municipales fue adjudicado a deloitte entonces eso también es preocupante y en tercer lugar porque

que se han conocido resultan evidencias de que había una relación de confianza impropia entre los gestores públicos y las empresas que han sido sancionadas pero es que además también hay otro punto de gravedad importante y es que en esta trama se han visto implicadas

relevantes quiero resaltar por ejemplo sabin azua que es hermano del expresidente jon azua ha sido multado por formar parte del cártel de las consultoras como administrador

y claro yo no sé por ejemplo si conoce el lehendakari que después de que

colocarse a la señora alba urresola al frente de la autoridad vasca de la competencia tres semanas después en dos mil diecisiete

el plan estratégico de la propia autoridad vasca de la competencia

por esto y por otras cuestiones yo creo que esto merece realmente una investigación muy

ya he explicado que hemos acreditado como tampoco las iniciativas que vamos a votar y que también ha señalado en todo caso sí querría subrayar que el procedimiento de la cnmc no ha concluido

su resolución a la junta consultiva de contratación pública y que cabe interponer

en todo caso el gobierno vasco va a mantener una actitud de prudencia para no señalar culpables cuando el procedimiento sigue abierto una actitud de colaboración para

una actitud de transparencia y buen gobierno para tratar de evitar cualquier tipo de irregularidad una actitud

el gobierno vasco reitera el compromiso con las buenas prácticas en la contratación pública y con la aplicación estricta de la legalidad vigente

egun on lehendakari han pasado dieciocho meses ya desde las elecciones generales en los que el papel de su partido y la actuación de su gobierno han sido claves para mantener al presidente sánchez en la moncloa donde el pnv le puso tres años gracias a ustedes los españoles contamos con el peor gobierno en uno de los peores momentos de nuestra historia porque ustedes nos cuentan nos venden

nos va bien a los vascos la relación de su gobierno con el señor sánchez también parece obedecer a esa lógica pero todos sabemos que cuando a españa le va mal a los vascos nos va a peor aunque al pnv le vaya bien o se dé por satisfecho a veces los hechos desmienten tanto idilio

a la de nuestros desatinos domésticos esta misma semana pensemos en azpeitia en el paradero del proyecto estrella en torno al hidrógeno

y que los incumplimientos de su socio las expectativas defraudadas afectan

clave para nuestra recuperación en nuestra tierra y para la superación

yo le pregunto lehendakari cómo valora la relación con el señor sánchez y los sucesivos incumplimientos pese a las expectativas creadas eskerrik asko iturgaiz jauna

ya que no quiere entrar en el tema a pesar de la pérdida de riqueza de la fuga de inversiones

vasco que tenemos mucho más satisfecho que nuestros hosteleros por ejemplo que se

con retrasos de labi y esperan que hagan caso de lo que nosotros hemos pedido ampliando horarios y que haya más comensales por mesa pero no entiendo comentarios suyos

a la relación que pueda tener con el presidente sánchez con el cual usted

porque solo recibimos desaires desaires sí se hace fotografías con él si hablamos de la sanidad mire si hablamos de la sanidad y la gestión de la pandemia como ya vimos hace dos semanas ninguneo político hacia usted allá se las compongan las comunidades autónomas

si hablamos de empleo y esfuerzos para la recuperación de las familias ahí está el regateo en torno al ingreso mínimo vital la propia señora mendia

para poco menos que una encomienda de gestión sin medios materiales si hablamos de futuro de reactivación de fondos europeos ya lo saben más de lo mismo castillos en el aire pasan los meses sin noticias y sin concretar nada y si hablamos de inversiones de infraestructuras ahí tenemos la tomadura de pelo del tren de alta velocidad menos corazón y más cabeza lehendakari

en dos mil dieciocho lo recordará el compromiso del señor rajoy gobierno del partido popular era dos mil veintitrés hoy vamos por el año dos mil veintiséis y sumando un año de retraso por cada año de gobierno del señor sánchez un verdadero record

los vascos con la apuesta del pnv por los gobiernos frankenstein de incumplimiento en incumplimiento

un lastre para la recuperación económica la estabilidad política o la proyección internacional de españa

se lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir a nosotros también en el país vasco nos va mal es responsabilidad suya de su gobierno de su partido que el señor sánchez esté

que no van a poder evitar las consecuencias de una complicidad

si fueron ustedes artífices de la llegada al poder del señor sánchez quizá deban irse planteando contribuir al fin de un ciclo lamentable el interés de los vascos pasa por poner fin
al ciclo de desatinos y desaires del señor sánchez en la moncloa eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz podría caer en lo jocoso pero no creo que me corresponde en todo caso sigo sin entender si es al pnv o al gobierno a quién se dirige mire yo he primado siempre la relación institucional

tanto con el partido popular como con el partido socialista y esta relación responde principalmente a tres elementos troncales las relaciones sectoriales

mi valoración es que en los dos primeros apartados con más o menos dificultades solemos avanzar en relación al tercero el incumplimiento voluntario ha sido una constante hasta enero del año dos mil diecinueve señor iturgaiz cuando el gobierno español en esa fecha tras propuesta por parte del gobierno vasco aprobó por primera vez

por cierto no le oculto mi preocupación por que un mes después de ese acuerdo ustedes con el impulso del senador iñaki oyarzabal presentaron en el senado

y no oculto mi preocupación por que ustedes aquí en el parlamento vasco afirmaron solemnemente que el estatuto está cumplido

lo mismo mire mi valoración de la relación actual con el gobierno español está muy condicionada por la lucha diaria contra la pandemia la dimensión y la relevancia de esta cuestión obliga nos obliga a todos y todas aun con las discrepancias conocidas

y en ese sentido valoro los avances que nos han permitido acordar cuatro transferencias pendientes en la comisión mixta del pasado diez de mayo es un paso positivo

esperamos también poder encauzar desde la relación bilateral el acuerdo y la colaboración tanto en la gestión de las ayudas directas como de los fondos europeos

nuestra desazón ante las dificultades para acordar los términos de la aplicación del ingreso mínimo vital en euskadi pero seguiremos trabajando para que se cumpla este acuerdo

nuestra determinación es mantener abierto el cauce de la relación bilateral con una auténtica voluntad de acuerdo la responsabilidad institucional es seguir avanzando paso a paso en la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad

digna de ganarse la vida ellos no son culpables de ese edén que ustedes les pintan y que sea todo menos un paraíso por eso me gustaría enfocar bien mi pregunta

por su competencia por parte de las diputaciones forales y los servicios sociales del conjunto de las administraciones y además estamos muy interesados en lo que pueda ser

en la que además de menores no acompañados también tenemos la preocupación por lo que es el tránsito hasta los veintitrés años

solidaridad vasca que vengan aquí a lograr su sueño y es en el empeño de promocionar una falsa realidad donde radica buena parte de su culpa porque la verdad es bien distinta y los casos de éxito son anécdotas aunque sus medios se empeñen en mostrarnos

el itinerario de estos jóvenes suele ser otro permanecen durante un tiempo en centros de acogida

otros no se benefician de nuestro sistema de atención social y cumplen los dieciocho años y salen a la calle con poco más de lo puesto atención para después condenarles al olvido eso sí después denunciamos que hay barrios que se convierten en guetos perseguimos a quienes intentan ganarse la vida vendiendo lo que sea advertimos a nuestros hijos e hijas de que tengan cuidado en determinadas zonas porque nadie garantiza su seguridad

la comida y el cobijo no son negociables sin comida y sin cobijo no hay vida posible y si careces de un trabajo para conseguir el dinero necesario si careces de esas oportunidades que creías tener en el dorado

y esa carencia de oportunidades sí es responsabilidad suya que son ustedes quienes manejan el dinero de todos soy consciente de la responsabilidad personal de cada individuo pero en este caso es incluso mayor la responsabilidad de quien ofrece lo que no puede ofrecer ni siquiera a los ciudadanos que le votaron

la dura cara de la realidad no pierden oportunidad de apuntar con su dedo acusador a quienes décimos lo que pensamos como lo pensamos a quienes defendemos una inmigración legal y ordenada y acciones concretas en el lugar de origen vox no alimenta las mafias no anima a miles de personas sin recursos a cruzar el sáhara y a malvivir

no les ofrece el dorado en un país en el que dos de cada cinco jóvenes no tienen trabajo

esa es la responsabilidad de quienes gobiernan de quienes mandan ustedes exprimen y mienten después ponen su mejor cara ante sus medios de comunicación y asunto resuelto

para que la opinión pública diga lo que de verdad no décimos por supuesto que estos niños y niñas que ustedes acogen en el país vasco a un módico precio no son delincuentes ustedes les condenan a delincuencia por no ofrecerles alternativas razonables de futuro

recordarle que muchos de estos niños son buscados aún por unos padres desesperados

ustedes hablan prometen y no hacen incumplen después ellas han de buscarse la vida como puedan como ustedes les dejen y ahí empiezan los problemas que todos sabemos que son reales ocupación tráfico de drogas delitos de mayor o menor gravedad todo eso que no vamos a ver en sus medios de comunicación pero que todos sabemos que suceden

ofrezca solo lo que de verdad puede ofrecer y deje de vender buenismo y propaganda

injusto para con las instituciones para con los medios de comunicación para con las asociaciones del tercer sector social que trabajan y trabajamos con los menores no acompañados

el verdadero fundamento de lo que es su planteamiento la estigmatización de los menores no acompañados en todo caso mi postura personal política e institucional es anteponer el compromiso ético y humanitario considero una obligación de las instituciones públicas atender a las personas que migran en búsqueda de un nuevo futuro esto es un compromiso básico

es además un compromiso compartido en euskadi entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales y de hecho en enero del año pasado suscribimos el pacto social vasco para la migración

en este sentido hemos propuesto una política europea común basada en la corresponsabilidad y concretada en la propuesta a hacer por todo ello la postura del lehendakari y del gobierno vasco va a ser

y maximizar la colaboración entre todas las instituciones y asociaciones para responder de la mejor forma a esta realidad como ayer lo volvió a hacer salvamento marítimo humanitario aita mari

tienen derechos y obligaciones que deben ser garantizados su acogida tiene una dimensión ética democrática que define la capacidad de solidaridad y civilización de una sociedad usted con su actitud y sus palabras está cuestionando que se acoja a jóvenes y menores que han llegado y se encuentran en una situación de extrema necesidad

es cierto que no tenemos capacidad para acoger a todas las personas pero sí de desarrollar una política de acogida común y acoger a cuantas podamos no me gustaría encontrarme señora martínez en la situación de la junta de andalucía que ve condicionada la gobernabilidad por la presión de su partido en contra de una ayuda básica humanitaria y una acogida a personas en grave riesgo de vulnerabilidad nada tiene que ver con lo que usted ha dicho nuestro compromiso es generar políticas comunes y de cooperación

de doscientos jóvenes y menores que se encuentran en estos momentos en ceuta euskadi siempre ha sido una sociedad solidaria ante las situaciones de sufrimiento y ha actuado

y vulnerabilidad nos sentimos orgullosos

un pueblo que ha sido migrante por diversas causas no sé si la parte de la sociedad que usted representa se ha visto en tesitura de tener que abandonar el estado

que generan miedo con argumentos falsos y cargados de mensajes

vamos a actuar con discreción con unidad con responsabilidad y colaboración plena con el tercer sector social eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

que ese debate este anclado en sólidas bases científicas académicas de experiencia y no actuar como hemos visto demasiadas veces estos meses según la conveniencia mediática

a los datos en estos dieciséis meses la respuesta institucional ha sido demasiadas veces un permanente ejercicio de cruzar los dedos para que esto

sin acercarnos a los objetivos marcados y sin plantear ningún plan estructural de cara al futuro gabezia egiturazkoak

estamos y seguimos estando ante un reto mayúsculo y es responsabilidad nuestra que la respuesta esté a la altura eta

hobetzen jarraitzeko siguiendo con la evaluación

el importe de los recursos económicos destinados a dar respuesta a la crisis de la covid mire las ayudas directas y gastos extraordinarios presupuestarios de las instituciones vascas ascienden

además se han aprobado medidas fiscales avales y prestamos garantizados para ayudar a las familias y empresas valorados en otros dos mil novecientos veinte millónes estos dos años por lo tanto las instituciones vascas hemos movilizado

evaluación sanitaria y haciendo referencia también a lo que usted ha mencionado el departamento de salud ha comenzado un trabajo de evaluación independiente de la gestión de la pandemia encargado a la universidad pública vasca señora iriarte esta tarea se encomendó a la upv hace seis meses se han realizado ya una veintena de reuniones de trabajo en las que han participado personas profesionales del ámbito sanitario y de la salud pública de euskadi que han estado implicadas en la respuesta a la pandemia

extraer lecciones a partir de una valoración objetiva así se están analizando los siguientes criterios de evaluación de las políticas públicas pertinencia efectividad eficiencia sostenibilidad y transparencia esta es la evaluación del trabajo realizado a lo largo de estos catorce meses una evaluación permanente

y hemos contado con una hoja de ruta y contamos con una hoja de ruta en una situación que seguimos manteniendo como es la de emergencia sanitaria

en el plan bizi berri hemos contado con una evaluación permanente de la actuación sanitaria y socioeconómica hemos solicitado a la universidad pública vasca

entiendo que hacer caso omiso de esta mención al estudio encargado por la propia institución que presido y

a parecer que nunca para ustedes nada es suficiente y además ustedes olvidando las urgencias demandas y necesidades del presente nos interpelan sobre las bases del modelo de gobernanza futuro bueno pues nosotros seguiremos trabajando acepto el reto ahora bien deberá usted aceptar

de las decisiones usted elude la cuestión del fin del estado de alarma y sus consecuencias e insisto en que

usted elude la realidad de una alternativa jurídica que pudiera ofrecer una respuesta a una pandemia global y reitero que este no es un problema local

un problema que antes o después nos está afectando a todos por igual usted también elude que este parlamento está tramitando una proposición de ley de medidas anticovid usted habla de promover un ejercicio colectivo sin precedentes y por qué no comienzan por ustedes mismos esta ley o esta proposición de ley que anticipa el futuro

esta proposición de ley es una apelación directa para convertir las palabras en hechos los discursos en realidades las críticas destructivas en constructivas beraz

el liderazgo no es así no lo entiendo así

resultado de un mando vertical tiene que ser capaz de crear y abonar un campo que genere sinergias y

se comprometa con lo que se está haciendo y yo creo que eso desde luego daría muchos mejores resultados en una situación de crisis como la actual y sobre todo en el momento de tener que dar respuestas a muchas cosas yo desde luego sí miro al futuro

no han apoyado ninguna medida del gobierno vasco ustedes han utilizado la pandemia como arma arrojadiza contra el gobierno vasco yo no recuerdo una palabra de ánimo

y ni siquiera lo voy a mezclar con las acusaciones y pretensión de reprobación a la sailburu su verdadero ejercicio colectivo ha sido criticar todo eso sí

pero la realidad es que su aportación real está vacía

reitero este mes la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública ha hecho público su informe

ha hecho público su estudio este mes la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales

consejeros consejeras señorías bien

lehendakari últimamente usted suele comparecer los jueves antes del pleno ante los medios de comunicación y suele concretar cosas por eso ahora le pedimos que concrete también qué va a pasar en esta sesión parlamentaria con los horarios con los grupos y que lo haga hoy aquí ya sabe que desde distintos sectores

que se comiencen a ampliar los horarios de hostelería el número de personas que puedan sentarse juntas en la mesa o el hecho de que se abran txokos sociedades gastronómicas

alguna comunidad vecina usted es el máximo responsable del plan bizi berri el presidente del labi y nos puede decir qué va a hacer qué medidas piensa adoptar en relación con ese desbloqueo hay que decir una cosa los establecimientos de hostelería en euskadi desde luego bajan la persiana hasta tres horas antes que en las comunidades vecinas

y por eso le preguntamos lehendakari cuándo tiene pensado tomar la decisión de desbloquear las restricciones de la hostelería y de las sociedades gastronómicas

en el país vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

y miembros del gobierno que puedan ser abordados por los profesionales de los medios de comunicación que están aquí a la entrada del parlamento

su caso y quien decide la firma sí del decreto soy yo pero en base a los criterios y a los dictámenes de la comisión científico técnica del consejo asesor del labi
y esto todavía está pendiente de cara a los próximos días eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

tendrá algún criterio habrá ido estudiando el tema usted preside ese órgano le irán diciendo y hablarán de esas cuestiones antes de que haya que tomar esas decisiones señor lehendakari cantabria castilla y león navarra la rioja abren ya hasta la una de la madrugada hay sitios donde se puede compartir mesa

señor lehendakari parece el labi de nunca jamás para muchas personas en este país para hosteleros usuarios

denuncian sectores afectados el agravio que existe con las restricciones aquí y las menores restricciones en otros

estamos asistiendo a una colección de desencuentros entre el sector y la administración y han sido varios los ejemplos ahora es el momento de que vaya mejorando el panorama laboral de muchos establecimientos turísticos hosteleros recreativos en este país señor lehendakari el labi es importante pero este parlamento es más importante por eso

le preguntamos qué va a proponer el lunes en el labi en relación con las cuestiones de los horarios de los grupos en nuestros locales de hostelería qué va a proponer en relación con las sociedades gastronómicas dos horas de margen

mucho dinero el que está en juego para la hostelería y para el turismo como también lo es aumentar el número de comensales

y se están aproximado también a la normalidad como trataremos de hacerlo nosotros y los hosteleros

han cumplido cumplen con las normas y las medidas de seguridad sanitaria y se han comprometido desde el principio con el control y la hostelería

o dice usted lo contrario supongo que además ya lo tienen bien comprobado por eso mismo lehendakari qué medidas va a tomar el labi el lunes en relación con este tema

que no tengo le recuerdo señor barrio que seguimos en una declaración de emergencia sanitaria emergencia sanitaria por mucho que haya decaído

autónomas y la conclusión es clara mire las medidas regulatorias aforos y horarios han sido similares a las de otras comunidades en situaciones sanitarias homogéneas los cierres de la hostelería han sido más prolongados e intensos en otras comunidades

alguno entre los afectados pone como modelo de hoja de ruta y euskadi ha sido la comunidad con más apoyo económico institucional al sector de la hostelería comercio y turismo ciento setenta y nueve millónes en ayudas directas adicionales y estímulos de consumo

primera constatación los cierres a la hostelería se han aplicado en todas las comunidades y en todos los países de nuestro entorno incluso con más severidad que aquí

la evidencia científica y los datos internacionales y del gobierno vasco en relación a espacios interiores como los que corresponden a los ámbitos a los que nos referimos confirman el riesgo que representa la interacción en interiores con estancias prolongadas y uso intermitente de la mascarilla la aplicación de las medidas alineada con las evidencias científicas señor barrio y con las recomendaciones y directrices de las instituciones internacionales y estatales le invito a usted

publicadas el catorce de agosto pasado principalmente y el veintiocho de octubre

sobre el impacto en los interiores de los locales de hostelería o documentos de síntesis de diferentes estudios internacionales vamos a seguir analizando la situación día a día adoptando las decisiones con equilibrio y tomando medidas soportadas en las recomendaciones de las autoridades sanitarias

y hay un cómo el cuándo es relevante la tasa de incidencia acumulada era de quinientos cuarenta y tres

en una semana el cincuenta por ciento de la ciudadanía habrá recibido ya una primera dosis de la vacuna estamos cumpliendo las previsiones y la situación sí está mejorando pero seguimos en emergencia sanitaria

se ha visto ralentizado en todo el estado el fin del estado de alarma ha anulado prematuramente medidas preventivas es clave no adoptar decisiones de modo prematuro muy especialmente en los espacios que los informes señalan como de alto riesgo lugares cerrados con menor ventilación de encuentro con personas diferentes y con uso de mascarilla no permanente en todo caso reitero la comisión científica técnica del labi aportará su dictamen y el lunes adoptaremos las decisiones de manera compartida
y no solamente en lo que respecta al sector de la hostelería eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

grafiko bat indicador de electromovilidad aquí nos aparece

el estado español está a la cola de la unión europea incluso si dejamos fuera a los países bajos y noruega que evidentemente tienen unas condiciones

pero países como alemania francia reino unido la propia media de la unión europea está muy por encima del estado español en cuanto al indicador de electromovilidad que mide tanto la penetración del coche eléctrico como el despliegue de la red de recarga y si vemos que el estado español está retrasado con respecto a europa vemos que en la media del estado español el país vasco está todavía por abajo

pero los demás están creciendo muchísimo más lo que significa que la distancia se agudiza y los últimos indicadores del primer cuatrimestre de dos mil veintiuno indican que se crece

en el estado español y en el país vasco pero se crece de una forma decidida

el coche eléctrico hasta alcanzar cuotas entre eléctricos y eléctricos enchufables

en el ocho y nueve por ciento cifras que duplican o triplican las que tenemos aquí frente a ello el gobierno vasco ha puesto en marcha una iniciativa en el ámbito de la automoción que es el plan renove un plan renove que yo creo que es un compendio de todos los problemas que este gobierno manifiesta a la hora de hacer las cosas

en el sentido que se ha anticipado su presentación y lo que ha provocado es precisamente la parálisis de las ventas en segundo lugar es un plan escaso de fondos con apenas cinco millónes

no responde a ninguna estrategia ni de sostenibilidad medioambiental ni de apuesta por el coche eléctrico de hecho es un plan que no afecta a la compra del coche eléctrico al ser paralelo con el plan moves del estado español

en la práctica lo que el gobierno vasco está haciendo es algo inédito está subvencionando solo los coches contaminantes está subvencionando solo

y de diesel cosa que no están haciendo los países punteros

alemania o el propio estado español por otro lado tenemos una estrategia un plan integral de movilidad eléctrica

en vías de renovación pero que ya era en su momento un plan demasiado poco ambicioso cuyos objetivos se han cumplido a medias y que ha quedado radicalmente obsoleto

sino porque el desarrollo tecnológico y el despliegue del coche eléctrico en estos últimos tres años ha superado las previsiones más positivas que ahí se podían contemplar por tanto como esta tendencia se va a agudizar como a lo largo de los próximos años vamos a ver cómo se va a dar una equiparación real en precio por el abaratamiento del coste de la producción de las baterías

del coche eléctrico que va a ser más barato ya con ayudas todavía antes de que se abarate en términos reales de producción como el año dos mil cinco va a salir una normativa euro siete que probablemente sea aún más restrictiva y deje prácticamente fuera de juego a todos los motores que no tengan como mínimo una hibridación enchufable ni siquiera una hibridación convencional o ligera como todo esto va a mucha velocidad y nosotros nos estamos quedando rezagados y rezagadas le pedimos al gobierno

qué es lo que está haciendo y probablemente luego lo que le pidamos es que haga un esfuerzo para ordenar

al hilo de las necesidades de una nueva movilidad más sostenible que pase por la electrificación pero también por la apuesta por el transporte público transporte compartido y el transporte ligero

en qué plazos por eso hacemos hoy esta interpelación una nueva estrategia una estrategia integral de movilidad eléctrica que contemple el desarrollo y el despliegue y el apoyo a la compra y adquisición y al uso del coche eléctrico también que plantee con fechas plazos

ese aumento del uso del coche eléctrico que plantee la electrificación completa de todas las flotas públicas tanto de coches como de vehículos que puedan ser electrificados que

como asociadas indisolublemente a la electrificación y que planteé también el uso de medios

tanto convencionales como eléctricas fechas objetivos y presupuestos para ello señora tapia eskerrik asko casanova jauna

zuzenean lotuta dago gure sailari comentarle que ya en septiembre de dos mil diecinueve se comenzó

realizando un análisis de cómo nos encontrábamos en movilidad eléctrica

y también desde el punto de vista tecnológico para renovar la estrategia energibasque en cuanto a su aplicación

por qué para tratar de anticiparnos a las actuaciones que teníamos que poner en marcha públicos y privados de una forma intensa

usted bien dice analizamos las siete funciones principales analizadas y programadas en un vehículo vamos a decir tradicional en un vehículo de los que

y donde se encontraban las dificultades y cómo afectaba a nuestro tejido empresarial a nuestro tejido productivo todas las oportunidades y las dificultades que se

y se analizaron muchísimos aspectos comenzando desde las baterías terminando por los nuevos materiales que habría que utilizar si nos centramos en el vehículo eléctrico detectamos tres áreas en las que había

desde el punto de vista del propio vehículo eléctrico considerábamos el vehículo híbrido enchufable sobre todo porque el otro consideramos que ya no es un vehículo de transición el eléctrico puro basado en baterías o el eléctrico con pila de combustible dándole también esa posibilidad del hidrógeno en este aspecto

en cuanto a las infraestructuras de recarga a las que usted hacía referencia evidentemente qué puntos de recarga necesitamos de qué características de característica más de carga lenta más de carga rápida

esos sistemas de almacenamiento de carga cómo los poníamos en marcha qué subestaciones qué modificaciones de red necesitábamos para ello y también considerábamos más allá de la pura automoción

que también se utilizan en la automoción cómo la podíamos utilizar en los sistemas ferroviarios o en otros sistemas que también pudieran adquirirlos y ponerlos

lo que observamos es que desde luego en esos equipos de infraestructuras de recarga teníamos experiencia y nuestras empresas podían estar ahí bien ubicadas y que el sistema

como usted bien sabe y también el sistema de recarga rápida desde la empresa ibil también hay otros otras tipologías pero teníamos esa característica ya

en cuanto a las áreas y tendencias de desarrollo tecnológico dónde se encontraban nuestras oportunidades y dónde podíamos dar el mayor salto desde una perspectiva de futuro cómo podríamos aportar en primer lugar desde luego desde las mejoras de las baterías por qué pues tal como hemos comentado hace quince días estuvimos hablando de la iniciativa basquevolt bueno nuestra capacidad tecnológica en nuevas

en las baterías de estado sólido podía ser un elemento diferencial pero no obstante la experiencia que teníamos también en las de ion litio actuales podía ser un elemento a profundizar motores eléctricos creo que ahí tenemos muchísimo que hacer porque no lo hemos desarrollado en este momento

de los vehículos que están en marcha no dispone de ningún motor que está desarrollado en euskadi sabemos hacer motores eléctricos tenemos muchísima experiencia en ellos cómo podemos aplicar esa experiencia para poderla utilizar

tener una capacidad de penetración en el mercado muchísimo más importante que la actual y qué papel pueden jugar las redes eléctricas inteligentes que estábamos pensándolas para la absorción de toda la energía renovable también en el caso de que

bueno pues en el momento en el que la mayoría de los vehículos que estamos utilizando sean eléctricos o híbridos enchufables esos se carguen de forma nocturna las necesidades que va a tener la red y cómo la vamos a poder trabajar

cuáles eran las oportunidades que teníamos que detectar y cómo las íbamos a trabajar como usted bien decía en el pcti dos mil treinta además de identificarse las áreas importantes de la industria inteligente de energías

recordará usted que hay tres iniciativas tractoras transversales y una de ellas precisamente es la de la movilidad eléctrica que acompaña al envejecimiento saludable y a la economía circular

el eje de actuación sobre el cual tenemos que profundizar en estos momentos desde el punto de vista tecnológico dónde hemos estado trabajando y dónde se ven las

bueno recarga inalámbrica recarga rápida con almacenamiento puntos de recarga individuales pero también colectivos o integración de un contador cargador de vehículo eléctrico puro para gestión integrada de la demanda esos son los aspectos en los que se empieza a trabajar ya y se han definido como relevantes

adaptar precisamente la gestión de la demanda a la red que tenemos en este momento

que pueden ser extremas en determinados momentos cuando esos puntos de recarga están en la calle

integración de fuentes de energías renovables por supuesto y desarrollo de nuevos componentes para la electrificación por qué porque en este momento toda nuestra industria de componentes está muy centrada en el vehículo tradicional y necesitamos hacer la transición que se pongan a producir nuevos elementos

battery pack de esas celdas que estábamos trabajando necesitamos

componentes estructurales que hoy no existen caracterizar y optimizar precisamente la vida de las baterías la forma de recarga a introducir electrónica de potencia que nos permita hacerlo

trabajando ese sistema de tracción que nos va a permitir entrar en un nicho de mercado en el que no estábamos y por último introducir soluciones tecnológicas ya con

en el sistema además de actuaciones transversales que necesitamos en formación y capacitación

trabajadores trabajadoras como toda la parte más científica tecnológica tenemos que estar presentes en el ámbito internacional por supuesto e introducir aspectos de innovación no tecnológica como la regulación a la que usted hacía referencia que va a ser muy importante ya lo es en este momento pero a futuro y

globales de ayudas para introducir la movilidad eléctrica en todos los aspectos de una forma haciendo una transición adecuada pero haciendo que vayamos sin duda ese objetivo que nos hemos planteado con iniciativas vamos a decir relevantes que usted también decía se recogen en el

y algunas de las cuales me gustaría señalarlas en primer lugar

no me voy a repetir pero la iniciativa mubil en el territorio de gipuzkoa

de capacidad e infraestructuras de tracción eléctrica y de comunicación y de vehículo conectado perdón y vehículo autónomo y además la forma en la que se va a fabricar de forma inteligente

del nuevo vehículo por tanto tenemos diferentes iniciativas estratégicas ya en marcha después de haber hecho esa reflexión

de eve continuaremos en la segunda eskerrik asko eskerrik asko

lo que pasa que lamento que no nos hemos sentido muy bien a la hora de entender el enfoque de lo que hoy le estaba interpelando a usted la verdad es que

a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones su respuesta me ha parecido extremadamente interesante y creo que aporta mucha información relevante pero creo que no ha estado centrada en aquellos aspectos sobre los que nuestro grupo estaba realizando esta interpelación

aprovechar la oportunidad que es a su vez una obligación que esta transformación de la movilidad supone para el sector industrial y por tanto buscar el mantener liderazgo que en este caso sí ustedes hablan muchas veces de liderazgos

hay un obvio liderazgo en la fabricación de componentes y en otros aspectos de la industria

desarrollar las capacidades que existen actualizarlas y adaptarlas a los requisitos que la nueva movilidad nos va a pedir entre ellas todas las de la electrificación

y no tener ni uno solo circulando por nuestras calles es verdad que esto es una cuestión transversal podía decirme no interpele al señor arriola pero bueno podía haber interpelado también a él

de la ley de cambio climático de la ley de sostenibilidad del plan de movilidad integral

sino que era la faceta de aplicación práctica de soluciones de movilidad eléctrica y sostenible

con el transporte público y colectivo con otras formas de movilidad y también con el automóvil y el automóvil lo que requiere en estos momentos es verdad que repetimos una y otra vez la cuestión es electrificar todos los automóviles que existan

pero que sí todos los automóviles que sigan circulando después de una revisión en profundidad del sistema de movilidad que dé centralidad

los que queden que sean eléctricos y eso requiere una proactividad por parte del gobierno porque no crea que en otros países no se están adelantando porque sí hoy mismo

hay un buen plan moves en cuanto a su dotación económica y él se quejaba de que faltaba agilidad en la concesión de esas ayudas

así como el gobierno francés cuando apoya el coche eléctrico sabe que en francia

y en alemania preferentemente coches alemanes todos estos planes se hacen con una intención se hacen con una intención que es la del desarrollo de la industria porque nosotros

pero sobre todo somos fabricantes más transversales de componentes

pero lo que no podemos decir es aquello de que electrifiquen ellos y nosotros aquí fabricamos coches eléctricos pero que electrifiquen ellos y que hagan planes para el desarrollo del coche eléctrico ellos

dos apoyos fundamentales por parte de los gobiernos uno apoyo a la

y dos apoyo al despliegue de una red de carga en diferentes niveles de potencia como usted planteaba que haga que tener un coche eléctrico no sea una aventura a día de hoy el coche eléctrico aunque esto no se suele decir el coche eléctrico

que el coche convencional pero a lo largo de todo su ciclo de vida de la misma forma que las emisiones tenemos que medirlas de un coche eléctrico también en su proceso de producción también el gasto tenemos que medirlo en su consumo ya es más barato pero evidentemente una inversión inicial que es una barrera que ustedes no pueden complementar el plan moves pero que podrían apoyar por ejemplo dando bonos de carga o por ejemplo

doméstica del punto de carga por ejemplo y luego está la cuestión de la red y lo que tiene que existir es un plan de despliegue de red que haga compatible el volumen de vehículos que se quieren vender y los niveles de vehículos que queremos vender

y esa era la pregunta o esa era la cuestión fundamental que le queríamos hacer

que están esbozados y que están puestas las bases pero que falta afinar en cuanto a su concreción y a su horizonte temporal volvía a decir que en el next generation por ejemplo hay dos proyectos relacionados con la instalación

lo que este gobierno tiene que tener es un planteamiento de cuántos coches va a haber al final de la década eléctricos

y qué tenemos que hacer como gobierno para que tenga una red de recarga que le permitan hacerlo hortik goaz

a que todas las emisiones de ce o dos que tenemos en este momento nuestro parque de vehículos es el más antiguo o uno de los más antiguos que existen en este momento a ser

no cero es cierto pero estamos consiguiendo reducir emisiones de ce o dos vehículos eléctricos usted conoce el moves bigarren tiene un presupuesto todavía de cuatro millónes y medio de euros

vehículos eléctricos como turismos camiones furgonetas y demás sino implantar infraestructuras de recarga por tanto ya está ahí al sistema de prestamo de bicicletas eléctricas y

en este caso además de adquirir vehículos eléctricos va infraestructuras de recarga el patime que es un programa de ayudas a inversiones en

dos millónes de euros adquirir ciclomotores vehículos pesados y material móvil en este caso se incluyen además

además se instalan ayudas de hasta el cien por ciento para

se impulsa la bicicleta eléctrica existen estudios energéticos para flotas o proyectos singulares en ciudades o en determinados ámbitos

de lo que es la sostenibilidad energética también están en marcha en este momento no me voy a detener en ello el plan pavea también para la renovación del parque móvil con vehículos más eficientes y menos contaminantes para en este caso vehículos ligeros eléctrico sí pero también híbridos enchufables e híbridos no enchufables

y vehículos de gasolina o gasóleo que emitan por debajo de una determinada cantidad

donde se incrementa el número de vehículos eléctricos se fomenta la adquisición de taxis en este caso únicamente eléctricos también se apoya la implantación de sistemas de car sharing únicamente eléctricos también

en general en todas las administraciones públicas y en todas las empresas la adquisición de vehículos eléctricos se facilita en todas las licitaciones que se ponen en marcha por parte de las administraciones públicas que los vehículos sean eléctricos y en todas las ordenanzas municipales se estima oportuno

eléctricos por tanto el tema de la infraestructura de recarga considero tal como usted ha dicho que es uno de los elementos clave para poder llevar a cabo una electrificación de una forma intensiva y tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en una ciudad donde existen multitud de vehículos eléctricos donde la mayoría de las personas

cómo vamos a dar respuesta a las necesidades de carga porque no existen garajes colectivos y todas los sistemas de carga tienen que estar de recarga en las calles creo que es un elemento

en una ciudad y no se trata ya de tecnología ni de ayudas sino de cómo los ubicamos qué prioridad se les da y cómo vamos a proceder a realizar ese tipo de

pero que va a estar más asociada a cómo se implanta una batería que realmente pueda responder a ese sistema de recarga por tanto tenemos algunos programas ya en marcha conocemos al menos algunos de los problemas a los que tenemos que hacer frente algunas dificultades y

ese tipo de actuaciones para asumir las dificultades que tenemos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

en los últimos meses hemos asistido a no pocos despidos por parte de empresas muy importantes del

perfectamente además hay una incertidumbre en varios sectores importantes

dos mil veinticuatro lo que sí sabemos es que el gobierno está comprometiendo importantes cantidades de dinero en algunos proyectos de los que se ha hablado esta mañana

sin someterlos a un debate parlamentario y con en nuestra opinión una falta de transparencia al no haber presentado siquiera algo parecido a estudios de viabilidad económica

van ustedes tarde con el plan de industria nosotros pensamos que es urgente fortalecer el tejido pero hacerlo protegiendo los puestos de trabajo al mismo tiempo que se acometen los cambios necesarios para orientar la economía a los requisitos del futuro por eso queremos preguntarle qué acciones tiene previsto su departamento para revertir la destrucción real

eskerrik asko presidente andrea señor hernández tal como usted decía estamos en los últimos momentos ya de la elaboración del plan de desarrollo industrial e internacionalización veintiuno veinticuatro que confiamos que llegue a esta cámara antes

no obstante señalar que a pesar de que ese plan no se encuentra todavía finalizado el plan del dos mil veinte lo seguimos aplicando el programa de ayudas que se ha puesto

ambicioso en cuanto al número de programas y en cuanto a las actuaciones

actuaciones más de sesenta y tres programas en marcha con cuatrocientos veintitrés millónes de euros creo que son cantidades relevantes pero no obstante existen empresas en dificultades evidentemente usted ha hecho referencia a algunas de ellas quizá las conocemos por su mayor dimensión pero existen otras de menor dimensión con las mismas o mayores dificultades como consecuencia de la pandemia a las que también hemos tratado de poner en marcha actuaciones ad hoc que no se encontraban en ninguno de los planes industriales ni en el que estábamos elaborando ahora

durante toda la época covid el apoyo a investigación y desarrollo específico con aplazamientos y devoluciones de ayudas ya en marcha con

asociado a lo que es la pandemia covid el bideratu covid con aplazamientos en alquileres con programas de cobertura de excedentes en el sector agroalimentario y con programas renove y desde luego con todos los avales que hemos puesto en marcha por tanto creo que

estamos trabajando en ese momento y sí después le daré algunos datos más pero desde luego

de forma intensa con sus estudios de viabilidad económica no se preocupe por eso pero están presentados todavía
única y exclusivamente en el next generation estamos trabajando para que puedan ser una realidad eskerrik asko eskerrik asko

tapia andrea la verdad es que sobre el plan de industria

o bien no se ha cumplido o bien hay un oscurantismo total porque desde luego a nosotros se nos ha hecho muy complicado poder hacer una valoración del mismo porque faltan

muchísimos datos señora tapia

como país de perder la oportunidad de un solo puesto de trabajo le sonará esta expresión porque es suya del pasado fin de semana son cientos de puestos de trabajo los que se han perdido solo en los últimos meses

coincidirá usted conmigo entonces que demasiados lujos nos hemos permitido en estos últimos meses y a nosotros nos parece que al gobierno vasco

este asunto sí la hemos visto en cambio en los últimos días ocupada en cuitas políticas y la verdad es que nosotros no sabemos realmente si

porque no los conocemos aún pero tampoco sabemos si las empresas que están ya destruyendo empleo tienen cabida en dichos planes porque su gobierno no lo hemos visto hacer nada al respecto hace apenas usted a una pregunta de mi compañero david del grupo parlamentario afirmaba que el gobierno vasco ni lidera ni deja de liderar que son las propias empresas las que saben cuáles son sus necesidades

esta filosofía y esta política señora tapia la incertidumbre se está apoderando de muchas empresas y sobre todo de muchas plantillas de muchas trabajadoras y trabajadores

por lo tanto nosotros lo que le pedimos es que

y que ponga a las y los trabajadores también en el centro pensamos que usted está liderando su departamento a golpe de teleberri los grupos parlamentarios nos enteramos de los planes o por la prensa o por mediáticas puestas en escena

no solo beneficie el negocio de las empresas de lo que se trata es de asegurar el futuro económico y de vida de la gente del país y para ello la administración pública

las riendas la que tenga la dirección por lo tanto una política en la que no quepa esa expresión de que son solo las empresas y únicamente las empresas las que van de alguna manera a dirigir la economía y por lo tanto en nuestra opinión también el futuro de euskadi

estamos en la elaboración de ese plan y está en su última fase no obstante el plan

todas esas ayudas que hemos puesto en marcha son precisamente para ayudar a acompañar a atender y tratar de buscar soluciones en el caso de que las haya a aquellas empresas en dificultades

nuevos trabajos nuevas contrataciones y que se encuentran con algunas dificultades ese es nuestro objetivo

en el sentido de cuáles van a ser las herramientas de acompañamiento cómo lo tenemos que hacer cuál es la situación como le comentaba el señor casanova del vehículo eléctrico por ejemplo dónde están las dificultades y lo trabajamos de forma público privada evidentemente pero sin el sector privado que nos diga cuáles son sus capacidades dónde están las dificultades dónde están los gaps que tenemos que cubrir desde luego sería muy aventurado que la propia

trabajarlo de forma conjunta y establecer los mecanismos por parte de la administración que se hayan detectado que son necesarios y desde ese punto de vista alguno de los elementos

de este plan de ayudas que hemos puesto en marcha antes incluso de aprobar el plan de industria son las ligadas a algunos elementos que nos hemos encontrado durante la pandemia como pueden ser desde luego

como consecuencia de que los suministradores están alejados todavía lo estamos sufriendo en el sector de la automoción

no tengan que sufrir esas paradas en algunos momentos conseguir que algunas empresas del mismo sector puedan trabajar de forma conjunta se puedan dar fusiones adquisiciones todo aquello que sea necesario para hacer un tejido productivo

existen los planes han existido y usted no tenga ninguna duda que como todo el resto de los planes el de industria también será remitido a esta cámara porque cada vez que lo aprobamos lo traemos aquí eskerrik asko

azpiazu don pedro maría hace unos días se ha hecho pública una resolución de la

de hacer cumplir las normas sobre defensa de la competencia que es tan importante para no solamente lo que es

de un estado social y democrático de derecho esta resolución

una sanción importante a numerosas consultoras que o bien operaban en el país vasco fundamentalmente o bien tenían

en el país vasco ciertamente también operaban fuera del territorio de la comunidad autónoma y gracias a eso me temo que gracias a eso es porque finalmente ha habido un caso si se hubiese quedado aquí solamente en euskadi no lo sé dónde habríamos acabado pero eso es otra discusión que tendremos otro día

además de sancionar como digo a un número muy relevante de empresas y a sus directivos

trescientos diecinueve páginas a doble cara tengo otra un poco más trillada que esta y la verdad es que lo que se lee aquí es impresionante

hay una parte jurídica hay una parte yo creo que institucional y una parte política que yo creo que es la que compete tanto a este parlamento como a este gobierno

lo desarrollaré ahora en mi interpelación como digo aquí en esta situación en este caso y a la vista de los correos electrónicos lo que se deducen son varias cosas y una de ellas es que había una cierta connivencia

por lo menos con ciertas administraciones públicas del país vasco

señor azpiazu esto es una cosa muy seria y mucho me temo que esto acaba de empezar los correos electrónicos que aparecen reseñados en la resolución le vuelvo a insistir es que son tremendos y cualquiera que empiece a tirar de esos correos electrónicos que empieza a hilar antes

pero sí me gustaría profundizar en algunas cuestiones mire la contratación pública como usted bien sabe señor azpiazu es importantísima supone en el caso nacional en el caso de españa

y más o menos un veinticinco por ciento del gasto público en euskadi es bastante más lo que pasa es que más difícil de calcular porque el sector público alimentado con fondos públicos aquí o del que el gobierno vasco diputaciones e instituciones son parte

para y las administraciones son muy importantes para el desarrollo de este tipo de instituciones de empresas

insisto leyendo porque estos son hechos probados la resolución de la cnmc se puede recurrir es cierto se puede recurrir

brillantes juristas que le roba a la consejería de la señora garamendi

seguramente le van a aclarar mire esto a lo mejor un tema de forma eventualmente todas las resoluciones que han sido

el montante de la multa nunca ha sido porque se dijera ah no resulta que es que no llevaron a cabo estas prácticas todas han sido por lo mismo un tema de forma un defecto de forma

es que encima se redujo la sanción porque se dijo no no es que encima el gobierno vasco las instituciones públicas habían desarrollado un clima que hacía presagiar que las empresas no se estaban comportando contra el derecho y prácticamente ya dijo bueno es que encima le echamos la culpa a las empresas cuando es que el gobierno vasco en el cártel de empresas de comedores escolares

en primer lugar hay una cierta hay una connivencia señor azpiazu y esto es lo que es muy preocupante

que como se deduce de estos hechos acreditados es que ya las empresas cuando tienen que concurrir a cierto tipo de contratos públicos usted lo sabe muy bien pues hombre no se pueden adjudicar si no hay un mínimo si no hay al menos en algunos casos tres licitantes no tres empresas

las empresas se proponían y se repartían entre ellas con lo que se llaman las ofertas de cobertura y les proponían ya a la propia a las propias administraciones

esas empresas finalmente eran las que acababan estando efectivamente ahí y eran las ofertas de cobertura de esas empresas

en segundo lugar las irregularidades están muy extendidas esto

en parte probablemente para quitarse responsabilidad o para quitar responsabilidad al propio gobierno vasco es que esto no es solamente es que aquí son diputaciones son ayuntamientos son entidades públicas y esto

el hecho de que no haya una persona que sea pillada en una foto así espectacular llevándose un maletín de dinero en efectivo y huyendo y además con un antifaz en los ojitos

el paradigma de la corrupción oiga este tipo de contratación

pero vuelvo a insistir es que esto nos afecta a todos es que este es el dinero de todos es que es el dinero público que es de todos

y la labor del gobierno vasco y la labor de las administraciones precisamente es salvaguardar el buen uso de este dinero público los sistemas de control han funcionado decía el lehendakari esta mañana que bueno pues que está aquí que en ninguna de las instituciones que ha controlado las cuentas pues que luego ha destacado que hubiese ninguna irregularidad hombre lo ha hecho la cnmc de momento

y hombre si me está hablando de otras instituciones que fiscalicen las cuentas una cosa es fiscalizar las cuentas y otra cosa es fiscalizar los procedimientos de adjudicación de contratos hombre a estas alturas entiendo que para una pregunta corta de cuatro minutos no le va a dar tiempo pero usted ahora tiene mucho tiempo para desarrollar este tema espero que lo desarrolle pues como usted bien sabe don pedro maría que usted es un gran parlamentario que no se limite

pero bueno aquí somos libres todos un caso

el caso del programa de empleo es tremendo en dos mil quince una de las empresas que está sancionada

gana el concurso para llevarse el contrato de asistencia técnica seguimiento y evaluación del plan de empleo dos mil quince dos mil dieciséis otra vez la misma empresa queda acreditado por la cnmc que hubo aquí connivencia

y que se amañó amañó finalmente esta empresa lo logró amañar el concurso con la connivencia de la administración pero es que en dos mil veinte otra vez es que en dos mil veinte otra vez y recientemente se sigue contratando nos hemos enterado por la prensa que se sigue contratando con estas empresas

se sigue contratando a estas empresas y esto es lo grave y aquí sí tiene margen de maniobra el gobierno vasco

en lugar de asumir aquí qué es lo que tenía que hacer el gobierno vasco lo que tenía que hacer aquí es asumir el papel de defensor de la legalidad

e ir contra estas empresas e ir contra estas empresas investigar por qué ha sucedido esto y poner todos los remedios para que esto no se pueda volver a producir es que esa es la función que tenía que adaptar el gobierno vasco en cambio el gobierno vasco qué ha hecho se ha puesto de perfil se pone de perfil

y parece que es el defensor de las empresas parece que es el defensor de los cartelistas

esto no puede ser el lehendakari esta mañana ha hecho tres consideraciones

ha dicho bueno esto es una sanción a unas empresas privadas me imagino que eso lo trae usted también preparado es una sanción a unas empresas privadas con lo cual es

viejas conocidas y con muchísimo arraigo en euskadi pero bueno a empresas privadas dice no en segundo lugar

todos los contratos al parlamento con estas empresas para que los analice hombre solo faltaba los hemos pedido ya es que ya los he pedido yo algún otro grupo también una batería de preguntas solicitudes de información documentada

es que va a cumplir la ley efectivamente hombre solo faltaba pero es que aquí hay que hacer más

pero me gustaría preguntarle qué piensa hacer el gobierno vasco en esto cuál es la posición que piensa adoptar el gobierno vasco en esta situación tan grave y que insisto señor azpiazu don pedro maría esto no ha hecho más que empezar

señor gordillo efectivamente señor gordillo

y directamente a lo que del literal de su solicitud de interpelación se desprende

ni a este parlamento sino al estado y por otra parte que el dispositivo vasco para detectar estas conductas anticompetitivas y que se desarrolla a través de la autoridad vasca de la competencia funciona de manera satisfactoria y con la eficacia que debe por eso no puedo aceptarle en ningún caso la sospecha que ha dejado usted sobre la mesa de que si esto se hubiera analizado en euskadi pues quizá no hubiera ido a ninguna parte esto me parece absolutamente impresentable señor de ello se desprende en respuesta a su cuestión que lo que de esta administración depende seguiremos afinando nuestros mecanismos de detección

de todos nuestros recursos ahora bien de la justificación de su solicitud se desprende y cito textualmente que la resolución de la cnmv relativa a este cártel de consultoras el texto de correos electrónicos de los que se podría deducir que el personal y o cargos de la administración tendrían o podrían tener conocimiento de este tipo de actividades esta afirmación me mueve a realizar algunas reflexiones que unidas a las que el propio lehendakari ha realizado hace un momento en este mismo pleno a la pregunta de la señora gorrotxategi sobre este particular

ante los hechos por los que me interpela en primer lugar es necesario recordar que fue la autoridad vasca de la competencia organismo autónomo dependiente de esta administración

que ha culminado con la sanción a un buen número de empresas de servicios de consultoría y a personas físicas que trabajan en dichas

porque a la vista de la cantidad de iniciativas parlamentarias planteadas al respecto parece ser que el gobierno vasco fuera la única administración afectada por las prácticas restrictivas

y nada más lejos de la verdad porque son múltiples las administraciones

como un cártel a este respecto por ejemplo si nos circunscribimos a la denominada red de colaboración del norte

de diversas administraciones desde marzo de dos mil nueve hasta marzo de dos mil dieciocho

y de esas ciento uno licitaciones únicamente veintisiete licitaciones corresponden

el resto de licitaciones se refieren a una múltiple variedad de entidades públicas

ayuntamientos y entidades dependientes de los mismos como de otras comunidades autónomas tales como por ejemplo el ayuntamiento de santander el servicio cántabro de empleo la sociedad regional de turismo de cantabria la junta de castilla león o la agencia de desarrollo económico de la rioja pero además la resolución de la cnmc también acredita la afectación a setenta y dos

en las zonas de andalucía baleares canarias castilla la mancha castilla león cataluña ceuta melilla comunidad valenciana extremadura la rioja madrid

en algunas comunidades en las que ustedes también gobiernan

en tercer lugar ante la reclamación de una apertura de investigaciones al respeto es necesario recalcar que las actuaciones investigadas por la cnmc no son las licitaciones tramitadas

sino las prácticas concertadas por dichas empresas para ofrecer coberturas ficticias en el marco de dichas licitaciones públicas unas licitaciones que en el caso de ser de las promovidas por el gobierno vasco fueron en su momento fiscalizadas

como el tribunal vasco de cuentas públicas órgano supremo que depende precisamente de este parlamento

de su investigación la cnmc ha realizado decenas de requerimientos de información

licitadoras en relación con los procedimientos que fueron alterados y con carácter general la actuación de las diferentes administraciones públicas afectadas

por lo tanto no hay justificación ni motivación alguna que ampare la apertura de una investigación en torno a unas licitaciones realizadas desde marzo de dos mil nueve

hace ya más de tres años y menos aún cuando el expediente de la cnmc no se desprende ninguna anomalía en el actuar administrativo

licitaciones incluso se ha llegado a solicitar la apertura de investigaciones

y las empresas sancionadas cuando tampoco queda acreditada dicha convivencia

también señalan que existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones

de prácticas contrarias a la competencia pero ninguna correspondiente al sector público de la comunidad autónoma ninguna de hecho

no se ha acreditado indicio alguno de connivencia por lo tanto tampoco hay justificación ni motivación alguna que ampare la apertura de alguna investigación al respecto en último lugar

de las medidas destinadas a evitar que se produzcan estas prácticas restrictivas de la competencia en la contratación pública no hay mejor fórmula que reforzar la transparencia y mejorar la regulación normativa de esta importante faceta

administrativo a este respecto merece la pena recordar

entre otras nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos ha implicado

del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía precisamente el procedimiento usado

investigadas por la cnmc dicho procedimiento muy utilizado en la práctica resultaba

y para paliar estas deficiencias dicha ley ha creado un nuevo procedimiento de adjudicación

abierto o simplificado en el que el proceso de contratación está concebido

para que su duración sea muy breve y la tramitación muy sencilla pero sin descuidar sin embargo la necesaria publicidad y transparencia

de licitación del contrato pero además también es importante que las administraciones públicas velen por la correcta

de la contratación pública y de modo especial por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y promuevan el seguimiento de las buenas prácticas con el fin de detectar irregularidades a estos efectos puede resultar muy útil la elaboración de manuales de buenas prácticas o guías que establezcan recomendaciones

en los procedimientos de contratación que permitan preventivamente evitar la posible realización de malas prácticas en los mismos y en este mismo ámbito podemos incluir

en su función de elaboración y propuesta de normas circulares instrucciones y recomendaciones que considere oportunas en relación con la contratación pública como así ha ocurrido por ejemplo con la recomendación uno barra dos mil veinte

en relación con los contratos menores tras la modificación de la ley de contratos del sector público operada por el real decreto ley

en resumen pues señor gordillo ningún atisbo de convivencia con las empresas sancionadas en el caso del sector público de la comunidad autónoma de euskadi respecto a las decisiones

o de las decisiones de los tribunales contenciosos cuando si mediara recurso por las empresas y personas físicas multadas

y adopción de medidas cautelares preventivas de buenas prácticas algunas de las cuales

gracias señora presidenta don pedro maría yo no sé si le ha fallado a usted el texto que traía o el subconsciente porque ha dicho que no hay convivencia

ese es el problema hombre me lo ha puesto a huevo no me diga que no ese es el problema mire sobre las cuestiones que ha comentado no voy a hacer porque ya me he adelantado como su jefe esta mañana le ha hecho spoiler pues entonces ya me he adelantado un poco a lo que pensaba que iba a decir asi que ya le he

tal mire hace falta una investigación es que hace falta una investigación

y es darle una oportunidad para que desde el gobierno vasco realmente realmente se inicie una investigación y que sea independiente y externa esto es fundamental

de la independencia en el mercado en euskadi es que hay que hacerlo señor azpiazu durante muchísimo tiempo y usted lo sabe el mercado de la contratación pública y otros mercados en euskadi eran mercados muy complicados para las empresas por otras razones pero es que ahora

muy competitivos no nos podemos permitir esto mire la sanción de la cnmc es que es hasta generosa con los cartelistas

harían propuestas de multas a los directivos estarían en la cárcel la multa tendría dos ceros más si esto fuera un país anglosajón es que aquí

pero es que esto es gravísimo insisto porque es el dinero de todos señor azpiazu las empresas ajustan su conducta al entorno social y económico en el que se desarrollan

no pensaba hacerlo digo don pedro maría es un hombre serio no me hará leer los correos pero bueno ya que me ha hecho leerlos se los voy a leer mire dos extractos por cierto hecho noventa y nueve

mire le leo un correo electrónico que envía el gerente de una sociedad pública a

consultoras al de una sociedad pública y le dice

te adjunto el borrador de prescripciones técnicas y las empresas a invitar

desde tu empresa pública es decir el pliego o sea ya

del pliego de condiciones y las otras empresas para que pareciera que había competencia es que ya lo mandaba una de las cartelistas esto es muy serio señor azpiazu

un correo en este caso de una alta responsable de una consultora a dos representantes de una institución pública de euskadi

las dos empresas a las que podrían enviar una invitación para el concurso

empresas llamémosla a y b son empresas que podrían presentar oferta si os parece bien os facilitaríamos los contactos

señor azpiazu es muy preocupante yo entiendo

de su equipo y el suyo personal por intentar que esto bueno bah es un tema aislado etcétera

pero hombre noventa y cinco contratos en euskadi eh es verdad que esto es una cosa es verdad que esto ha sido un terremoto que ha sacudido a toda españa pero el epicentro estaba en euskadi el epicentro estaba en euskadi noventa y cinco contratos en euskadi uno en la rioja uno en castilla y león uno en santander uno en cantabria

azpiazu en mire yo sé que es usted un hombre serio le tengo respeto le pedimos tres cosas le pido tres cosas

que se recoge el sentir de la oposición primero abra una investigación interna

y de verdad independiente y segundo persónese como gobierno demande por daños a estas empresas cartelistas que con sus prácticas

es que tiene que personarse tiene la obligación de personarse y en tercer lugar una pregunta va a seguir el gobierno vasco contratando con estas empresas

señor gordillo usted sabe que no hay ni connivencia ni convivencia

lo que pasa es que usted pretende embarrar no embarrar el campo político y divertirse un rato con esta cuestión que usted piensa que le pueden sacar rédito político y eso no dice mucho de usted como político

el mejor medio para evitar las conductas restrictivas de la competencia señor gordillo debe venir por una mejora de la

estas son las principales herramientas que pueden permitir una mejora en la contratación

unas investigaciones que son reclamadas simplemente con el ánimo de corresponsabilizar a las administraciones públicas en general

de unas determinadas empresas licitadoras tampoco se entienden

al consejero de economía y hacienda para dar explicaciones de un expediente sancionador

de los mercados y la competencia cuando el gobierno vasco lejos de ser parte en dicho expediente en todo caso habría de ser considerado como una de las víctimas del supuesto cartel

en tal sentido la pretensión de reclamar explicaciones al gobierno vasco sobre dicha cuestión en una interpelación

en mi opinión torticero de esta iniciativa de impulso y control al gobierno en definitiva

y al departamento de economía en particular con unos usos hipotéticamente impropios cuando no presuntos usos clientelares de la actividad contractual de la administración

tanto por el gobierno vasco como por el departamento de economía y hacienda

como usted ha hecho documentada en relación a las contrataciones del gobierno vasco

y realizar esta interpelación cuando esta información todavía no se ha facilitado al no haber aún concluido el plazo de la remisión pero claro

cuando reciba la información ya quizá le resultará políticamente menos rentable porque es ahora cuando esta cuestión está de actualidad eskerrik asko eskerrik asko

señor consejero hablamos ahora del sector aeronáutico un sector crítico que además está en una situación crítica y hablamos también del programa

el pasado día nueve de marzo desde nuestro grupo parlamentario le solicitamos información al gobierno vasco sobre los proyectos aeronáuticos que iba a recoger

el origen de esta iniciativa fue la importancia que se le estaba otorgando al sector dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia que estaba elaborando el gobierno de españa con el objetivo de acceder a los fondos del mecanismo

ante esta solicitud de información la respuesta por parte del señor consejero a la citada iniciativa llegó el día diecinueve de abril quiero hacer notar acaba de pasar un mes escaso

comillas no se contempla ningún proyecto en relación con el sector de actividad por

sin embargo observamos sorprendidos que el día diecisiete de mayo apenas un mes más tarde

le surgen como setas proyectos en el sector por valor de trescientos treinta y cuatro coma tres millónes de euros

qué ha pasado en este escaso mes qué ha cambiado por qué antes no se recogía en ningún proyecto y de repente han aparecido trescientos veinticuatro millónes y a ver si nos pudiera dar un poco de información sobre esos proyectos sobre los que tenemos escasísima información

se han producido avances significativos en cuestiones relacionadas con la gestión de los fondos europeos

una de las más relevantes es el real decreto ley treinta y seis barra dos mil veinte por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación transformación y resiliencia

con una clara orientación para poner en marcha inversiones transformaciones y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente neutras

circulares respetuosas con los límites impuestos por el medio natural y eficientes en el uso de los recursos en su artículo ocho plasma

son proyectos de carácter estratégico con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía señor gil lo que en diciembre se planteó desde el gobierno de españa como perte

a un ámbito de actuación españa ha definido en su plan nacional de recuperación dado a conocer en abril seis de los diez perte que tiene previsto lanzar

el programa vasco ha incluido proyectos que pueden ser incorporados a este perte de manera que nuestro sector pueda tener opciones de absorber recursos del mrr y generar riqueza y empleo en euskadi eskerrik asko

efectivamente en la actualización que ustedes han presentado aparecen cuatro proyectos cuatro proyectos del sector aeronáutico que ocupan entre los cuatro una sola página sin que podamos saber

ni con qué apoyos cuentan esos proyectos ni nada ni ninguna otra información

poco realismo poca información y mucha fantasía

ayudas por ejemplo para un proyecto dotado con cuarenta y dos millónes de euros para lanzar satélites desde foronda por si acaso alguien no me ha entendido lo repito para lanzar satélites desde foronda del que no sabemos oficialmente más que las tres líneas

señor consejero no es esto lo que necesita el sector aeronáutico que se está muriendo

y en esta situación esto huele a improvisación por todas partes a prisas por meter proyectos poco maduros en un sector que resulta crítico y que está pasando graves dificultades es decir a gestión de mala calidad que contradice de que aquí gestionamos mejor que los demás y aquí nos encontramos con una cifra de este importe nada más y nada menos que cientos de millónes de euros con una
página y con proyectos que tienen menos de tres líneas gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko

yo creo que carta a los reyes magos poca carta yo creo que la gente que lo ha hecho lo ha hecho con conocimiento pleno de lo que estaban haciendo

de diciembre se mantienen los ocho componentes que reflejan las prioridades de inversión

coherentes con los siete ámbitos emblemáticos señalados por la comisión europea así como por las diez palancas y treinta de componentes recogidos en el plan españa puede del trece de abril

sobre la necesidad de volcar los esfuerzos y los recursos en favor de la transformación y no tanto de la recuperación desde el convencimiento de que la transformación traerá la recuperación pero no necesariamente si se hace al revés todo ello nos ha llevado a dar

la transformación y que por su complejidad requieren de respuestas innovadoras y ambiciosas como los perte

agilizar todos los procesos por este motivo

como palancas transformadoras contamos con capacidades y proyectos relevantes

son capacidades científicas formativas tecnológicas industriales que euskadi viene desarrollando e impulsando desde la primera transformación socioeconómica del país

inexistente hace treinta años pero que hoy en día cuenta con un cluster y empresas tractoras

en enero a la manifestación de interés de programas de impulso de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial

y le adelanto que seguirán cambiando y este gobierno tendrá la suficiente cintura como para aprovechar cada nicho de oportunidad que se abra para nuestras empresas y

hortik galdetzea en cuanto a la tramitación

de enmiendas le vuelvo a decir y además le vuelvo a decir y le insisto con un tema que usted intentó

sobre la memoria de la universidad que sigue siendo desfavorable a la tramitación como universidad de este proyecto

le hemos pedido por escrito este grupo y otros grupos la información sobre la memoria presentada por los promotores de este proyecto al departamento y no está ustedes nos han respondido que tenemos toda la información pero nosotros no tenemos toda la información

del proyecto y además como pudimos ver en las comparecencias señalado por varios comparecientes de la tramitación de este proyecto de ley pues tengo y tenemos una sensación como si fuéramos una mera oficina burocrática de gestión de proyectos donde viene cualquiera con un proyecto que encima no tenemos toda la información y el único papel del parlamento es ponerle de aprobado o denegado creemos que la función de esta cámara sobre la política universitaria va mucho más allá de eso y sobre todo sobre este proyecto y también sobre el sistema universitario vasco y sobre el ecosistema universitario vasco galdetu nahi dizut

presidente andrea sailburuok eta martínez jauna en respuesta a su pregunta le informo de que el encaje de cualquier universidad con sede en la comunidad autónoma

está determinado por la ley tres barra dos mil cuatro de veinticinco de febrero del sistema universitario vasco y concretamente en su título octavo

universidades no públicas donde se especifican sus condiciones en el artículo ciento ocho su reconocimiento en el artículo ciento nueve los mecanismos de control en su artículo ciento diez y las características del profesorado en su artículo ciento trece

ekosistema nuestro ecosistema universitario se constituye de esta manera como un sistema cohesionado

aunando lo público y lo privado y así lo han demostrado y así lo ha apreciado la sociedad vasca

sobre en la mitad de la tramitación de este proyecto de ley que el gobierno vasco cambiara sus fondos

y que son sesenta y cuatro millónes de euros de dinero

yo le voy a decir a dónde van esos sesenta y cuatro millónes un ejercicio una usted la línea de puntos de las siguientes palabras señor consejero

capital que va para formación y desarrollo en tres áreas salud nuevas tecnologías y deportes o casualidad las tres mismas áreas que va a gestionar la universidad

público según lo que hemos oído en esta cámara por sus promotores y por otros representantes políticos hau da funts publikoen bitartez finantzatuko da eliteko

destinar esos sesenta y cuatro millónes de euros a hacer centro de alto rendimiento deportivo junto a la upv o junto a osakidetza y por qué hay que hacerlo con un proyecto privado que va a tener grados universitarios a ocho mil euros un colegio privado internacional en la ciudad de euskadi con más segregación escolar

upv a escasos metros por qué hay que financiar con dinero público

jauna el departamento de educación cumpliendo con la legalidad ha realizado los trámites requeridos para cumplir con la legislación vigente

por último me gustaría poner de manifiesto que si la postura de su grupo en lo relativo a la creación de universidades es la que usted traslada aquí resulta cuando menos sorprendente que no se recoja de manera expresa lo que usted está trasladando en el texto del borrador del real decreto que regula la creación y reconocimiento de universidades

que están acreditadas en el estado español eskerrik asko eskerrik asko

consejero miren el veintisiete de julio de dos mil dieciséis por decreto

bajo bidasoa en el apartado siete punto cinco el decreto en cuestión sobre el área de carácter estratégico de la bahía de pasaia se contemplaba la recuperación

para la ciudad y cito textualmente

se combina este ejercicio de ordenación de la bahía con el escenario planteado en el plan territorial parcial sobre la futura configuración de la red ferroviaria en el que se contempla al margen del horizonte de la posible adaptación parcial de la red de adif al ancho mixto la construcción

la resolución de los enlaces ferroviarios con el puerto y la posibilidad de futura deslocalización y minorización de la playa de vías de mercancías de pasai antxo

con plataformas logísticas de apoyo por lo tanto el gobierno vasco en dos mil dieciséis ya era consciente de la necesidad de la recuperación de espacios para la ciudad de pasaia así como de la minorización del uso de la playa de vías en cuestión mire

del ptp es este el espacio al que se hace alusión esto es

y estas son las vías de adif que se quieren recuperar

sin embargo el seis de marzo de dos mil diecinueve sale una noticia en el diario vasco en el que aparece la alcaldesa de pasaia con isabel pardo presidenta de adif y en la noticia pone que la alcaldesa ha conseguido que adif

sin embargo todos sabemos que adif está llevando a cabo una renovación de todas las estaciones que tiene en el país vasco por lo tanto la alcaldesa solo se ha sacado una foto con isabel pardo recibiendo la noticia de la renovación de la estación de pasaia pero no ha conseguido nada nuevo o nada que adif no estuviera dispuesto a hacer ya de antes no estaba dispuesto y además que estaba ya incluido en el ptp es decir

nada pues esa gestión se traduce como nefasta para los ciudadanos pues bien los vecinos que no conocían el ptp no tienen por qué hacerlo se juntan

tras una reflexión profunda de los vecinos presentan al pleno del ayuntamiento un proyecto similar casualidad al del ptp del decreto ciento veintiuno barra dos mil dieciséis que encima

de la ciudad izaskun gomez se compromete a negociar con adif en los términos del acuerdo plenario

espacios para pasaia en el tramo de la nmenos uno a su paso por la ciudad

de adif tengo que decir que esas vías en los últimos diez años solo

sí que es cierto que a día de hoy se han hecho una serie de cambios pero

y en enero de este año el viceconsejero de infraestructuras y transportes pedro marco y la alcaldesa se reúnen con los vecinos

en hacer esta nueva estación en la misma ubicación en la que ahora existe y les dicen que es una buena opción para la ciudad y que dentro de siete años cuando esté terminado el by pass de astigarraga gantxurizketa

y de recuperar terrenos para la ciudad además los vecinos

una petición de información sobre el sobrecoste que

acorde al ptp y lo que le dicen es que hasta que no se termine el proyecto de la estación tal cual está hoy en esta ubicación

vale hasta ahí todo bien sabemos también que el ptp no es vinculante para adif sino lo único que el ptp compromete es que los políticos tengamos que ir a negociar para alcanzar

pero también tenemos que citar que el gobierno vasco consigue que

adif invierta cuarenta y ocho millónes en el país vasco de los cuales tres

pero claro aquí parece que como los millónes llueven pues no pasa nada nadie se ruboriza al decir que vamos a gastarnos tres millónes de euros ahora para derribar una estación o para renovarla pero que luego dentro de siete años cuando ya está realizado el baipás astigarraga gaintxurrizketa

indica el ptp ya negociaremos con más adelante con adif hombre pues

porque dentro de tres años la voy a volver a tirar pues igual espero igual espero

que pueda acompañar a la instalación hasta dentro de siete años que se haya ejecutado el baipás

haré una nueva estación acorde al ptp además si el gobierno vasco

en pasaia con respecto a la construcción que tienen los vecinos el bloque de viviendas la nacional y los trenes la estación los trenes y el puerto y que es no hay más sitio por lo tanto es la única opción que tienen los vecinos de pasaia

que tanto se necesita hoy en día y mire le voy a hacer una reflexión qué es lo que sucede cuando

desde las administraciones aunque gestionamos el dinero de todos los ciudadanos no le demos importancia

y se dice alegremente ya se tirará dentro de unos años ya se renovará pues mire es normal que sorprenda y es normal que los vecinos se sientan escandalizados cuando realmente lo que están pidiendo es un lugar de expansión que podría

a día de hoy llevan diez años dos

abandonados ahí y lo que hacen es moverlos de un lado para otro pero esos vagones no salen de la estación por lo tanto dos vías sobran ahora se ha adaptado con el tema de las obras de la estación de donosti entonces lo que se ha hecho se ha hecho un apeadero del lavadero

hay cosas mucho más importantes para los vecinos que son

no hay bidegorris si ustedes han pasado por ahí es una zona como muy

muy desagradable realmente no es un sitio para expandirse no es un sitio para pasear entonces

en la interpelación la pregunta es qué motivos le llevan a no poner en práctica el punto siete punto cinco del ptp territorial parcial

qué le lleva a no poner a no llevar en marcha el ptp de pasaia porque en realidad sería

gracias señora presidenta señora larrea permítame que comience mi intervención haciendo

al ordenamiento territorial de euskadi y sus diversos niveles normativos como todos ustedes conocen

son los documentos que definen los usos y los criterios de desarrollo de las áreas funcionales en las que se ha dividido euskadi es el escalón intermedio las directrices de ordenación del territorio que comprenden el conjunto del país vasco

se establecen un conjunto de objetivos estrategias y recomendaciones que tienen como objeto consolidar procesos de ordenamiento en un ámbito territorial de forma integral por resumir los planes territoriales parciales de los instrumentos a través de los que se desarrolla la ordenación territorial del país vasco y concretan en cada

los criterios y pautas específicas establecidos en las directrices de ordenación del territorio

en los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico municipales

el plan territorial parcial del área de donostia san sebastián

se aprobó el veintisiete de julio del dieciséis como usted bien decía la interpelación que plantea usted

séptimo del ptp que establece el enclave territorial de la bahía de pasajes como área de carácter estratégico

de manera aplicable a todos los enclaves identificados con medidas de carácter estratégico el ptp dispone

infraestructural y o urbanística de carácter específico y orientativo así mismo y como acabo de señalar se determina que

se podrá llevar a cabo a través de los instrumentos de planeamiento urbanístico previstos en la ley del suelo es decir planes generales planes de compatibilización

etcétera además el artículo veintisiete referido al área de carácter estratégico de la bahía de pasaia establece de manera genérica la reordenación de la estación de adif en pasai antxo con la reversión de espacio libre para la ampliación en antxo

y el tratamiento de la barrera ferroviaria entre antxo y el puerto por su parte el artículo cuarenta y dos contempla que la ordenación urbanística deberá aplicar las determinaciones de carácter vinculante establecidas en el ptp y observar

presentadas en el mismo en paralelo y como me imagino que ya conoce el ayuntamiento de pasaia ha iniciado el proceso de revisión

aunque se encuentra todavía en un período muy incipiente dado que en marzo de dos mil veinte dio comienzo la fase de participación ciudadana elaboración del avance de dicho plan en este contexto

sobre la licitación de unas obras de reforma en el edificio de la estación de la localidad

llega esta interpelación sobre una supuesta intención por parte de este gobierno de no poner en marcha el plan territorial parcial en pasaia

ni esta administración esta maniobrando para evitar el desarrollo del ptp

ni el plan se está incumpliendo por parte de ninguna entidad

en primer lugar y como ya he apuntado será la ordenación urbanística la que deberá incorporar las determinaciones del plan territorial parcial

en el caso de determinaciones vinculantes no así en el de las recomendaciones aunque si estas no son recogidas

por el municipio en su redacción

establece una determinación vinculante para la ordenación urbanística de este ámbito de pasaia y por tanto deberá ser el propio municipio quien determine los contenidos de su nuevo plan general

del plan territorial parcial por otra parte no se puede considerar tampoco que las obras planteadas por adif

del plan territorial parcial estas obras consisten fundamentalmente

y seguridad de la actual estación de pasaia así está previsto construir un paso inferior entre andenes que dispondrá de ascensor y eliminará el cruce de viajeros

se va a sustituir además el viejo edificio de viajeros por uno nuevo que resuelva el desnivel existente entre el acceso y los andenes

protección de los viajeros se trata en definitiva de unas obras de adaptación de un espacio

público esencial a las necesidades actuales

desdeñar porque supone una mejora evidente en la calidad y las condiciones del servicio que oferta el operador ferroviario y porque estamos hablando de una red

por otra parte también me gustaría aclarar que en nuestro departamento siguiendo los dictados de la movilidad sostenible hacemos un planteamiento integrado de los diferentes modos de transporte y en este sentido consideramos que los diferentes medios deben convivir en la medida en que sea posible favoreciendo aquellos sistemas más respetuosos con el medio ambiente como son el ferrocarril

y fomentando además el impulso de la movilidad activa pero también tenemos claro que cuando existe controversia o desacuerdo entre estos siempre debe primar el interés general en todo caso

la vida de un plan territorial parcial es larga y como le he comentado corresponde a los planeamientos municipales la función

no me ha contestado porque en realidad se ha ceñido a decirme algo que ya era lógico ya sabemos lo que es un ptp ya sabemos en qué parte es vinculante y en que parte no es vinculante ya sabemos que el municipio tiene que desarrollar su pgo

hablando de algo mucho más profundo y es que si plantea y si está de acuerdo en el desembolso

en la renovación de esa estación en una ubicación en la que más adelante si se cumple el ptp

intención de cumplir ese ptp aunque tenga una vigencia de veinte años

más hacia el puerto lo que le estoy diciendo es que en vez de hipotecar a los ciudadanos de pasaia durante siete años o catorce o quince o dieciséis

esa inversión es ahora en este momento creo que habría que replantearse las necesidades

en una infraestructura de interés general como es el ferrocarril a su paso por pasaia lo que quiero decirle es que hay que gestionar hay que intentar que se gestionen bien los dineros y hace una obra para tirarla dentro de unos años

el descontento de los ciudadanos de los vecinos de pasaia que están pidiendo a gritos que necesitan un desahogo porque la zona en la que viven está tiene varias infraestructuras

el puerto que les impiden desarrollarse con serenidad en su ciudad lo único que yo ya sé perfectamente los ámbitos de acción que tiene el ptp pero lo que

a veces valentía para decir que una cosa

de la cual está careciendo en estos momentos gracias eskerrik asko larrea andrea arriola jauna zurea da hitza

señora larrea creo que le he dejado claro en mi primera intervención

del servicio ferroviario de la zona y no alcanzo a entender muy bien cuál es el objeto de su interpelación más allá de que sea el paso previo

ha dejado claro a la alcaldesa y al ayuntamiento de pasaia cuáles son las razones en base a las cuales no puede eliminar en el corto plazo una parte de la playa de vías de la estación y es que las razones de adif son que el futuro de las playas de la playa de vías

de la alta velocidad para mercancías a través del ramal astigarraga lezo gaintxurizketa que además

se utilizan esta playa de vías como apartadero de mercancías y trenes para no interferir en el tráfico ferroviario de cercanías ni en el de largo recorrido y además la vinculación

la vinculación logística a la actividad portuaria que hoy por hoy pasa por esta estación

que en estos momentos en la coyuntura actual de desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en el ámbito hacen inviable el plantearse

la reducción de la playa de vías y en ese sentido coincido

la alcaldesa y con el equipo de gobierno de pasaia

lo urgente y lo óptimo y lo urgente

y que no cumple con la legislación en la accesibilidad porque qué es lo que pretende usted que

que rechacemos una inversión de tres millónes de euros del estado en euskadi para la mejora de esta estación estamos hablando

entendido en su concepto más amplio con infraestructuras ferroviarias adecuadas cómodas modernas accesibles eficientes

un municipio que por cierto va a experimentar una mejora muy considerable en las prestaciones ferroviarias en los próximos años este pasado mes de abril hemos sacado a licitación la construcción de la variante ferroviaria del topo entre altza y galtzaraborda

incrementar las frecuencias de los trenes y llevarlas a los siete coma cinco minutos la nueva variante va a tener un impacto muy positivo sobre la traza urbana de pasaia

y a ello hay que sumar la disminución de las molestias por ruido que el soterramiento de los trenes de viajeros va a suponer para los vecinos que viven cerca de la vía

de esta obra se producirá a lo largo del mes de julio de forma que pueda empezar este mismo otoño asimismo tenemos previsto licitar este año

lo que nos permitirá encontrar una solución al transporte de mercancías a su paso por antxo además el departamento está trabajando

y el diseño de penetración de una red en ancho métrico al puerto de pasaia

y por supuesto en consonancia con lo que en materia ferroviaria plantea el ptp de donostialdea bajo bidasoa como ve

y esta legislatura está experimentando un fuerte impulso que redundará en una mejora de las condiciones de vida de sus vecinos por cierto también hemos conocido hace un par de días que adif va a empezar en otoño

que permitiría la entrada de trenes más largos en la localidad una obra cuyo convenio se firmó

y en la que se consideraba prioritario no solo no reducir la playa de vías

cree en la conveniencia de diferenciar los medios de transporte de forma que puedan buscarse puntos de encuentro siempre
sobre la base de la eficaz organización de los servicios ferroviarios y en base al interés general eskerrik asko

señor fernandez de betoño efectivamente el pasado mes de abril

entidad sin ánimo de lucro para la constitución de la fundación opengela

las cuatro intervenciones en fase de ejecución en este momento a otros puntos de euskadi en los próximos años la fundación trabajará bajo el liderazgo y la tutela del gobierno vasco

estarán acordados por este departamento y con los ayuntamientos en cuyos ámbitos se lleven a cabo los proyectos

el gobierno vasco no va a dejar en manos de nadie los proyectos de regeneración urbana sino que va a darles impulso a través de fórmulas de colaboración público privada

con mayor agilidad como sabe los proyectos piloto que están desarrollándose en estos momentos son cuatro

pero no nos contentamos con esto tenemos uno de los parques de vivienda más antiguo del sur de europa y no queremos dejar a nadie atrás en los procesos de rehabilitación

de la accesibilidad queremos replicar este modelo y llegar a nuevos barrios necesitados también de intervención de hecho como ya sabe hemos solicitado financiación europea a

para poder ampliar los fondos que tenemos actualmente en nuestros presupuestos todas nuestras intervenciones de regeneración tienen una dimensión multisectorial y comprenden actuaciones tanto físicas como de carácter social por eso

en cada ámbito existe una oficina de barrio que funciona como ventanilla única y sirve de apoyo

como en los administrativos contables financieros o de gestión para eso entre otras cosas

opengela para prestar este servicio y procurar tanto asesoramiento como acceso a las fórmulas de financiación

junto con el gobierno vasco es una organización perfectamente solvente y cualificada

en fin después de lo que ha comentado usted tengo la sensación de que en el fondo lo que les disgusta de verdad no es el preacuerdo que hemos firmado sino que

y la iniciativa privada puedan entenderse y trabajar de forma conjunta me temo que su desconfianza no tiene que ver con las condiciones de preacuerdo sino con sus prejuicios

la mayor parte de las administraciones ya lo están utilizando y se está impulsando en los planes de recuperación puestos en marcha

del mercado al servicio de los objetivos públicos por otra parte

en este acuerdo se prevé que pueden incorporarse al mismo otras organizaciones con intereses y objetivos similares

esté ubicada en pasaia donde intervendremos con una aportación de ocho millónes de euros esto

no es dejar en manos de nadie el proyecto sino impulsarlo para que llegue de forma eficaz a la ciudadanía eskerrik asko

buenos días de nuevo gracias presidenta y consejeras señorías bien le voy a hacer una pregunta sobre la denominada crisis de la segunda dosis

no se han dado por parte de las autoridades sanitarias explicaciones claras en relación al criterio de vacunación seguido para las personas de menos de sesenta años que recibieron la primera dosis de astrazeneca eso lo sabemos porque lo

el debate que hay entre la ciudadanía además innumerables expertos sociedades médicas y científicas la propia agencia europea del medicamento la organización mundial de la salud han certificado la conveniencia de inocular la segunda dosis de la vacuna de oxford a los que recibieron la primera dosis

la medida de trasladar la responsabilidad al ciudadano en relación con la discrepancia en lo relativo a desmarcarse del criterio gubernamental de suministrar la segunda dosis

esta es una cuestión que afecta a todos que nos afecta a todos y la verdad es que

de lo que es ese criterio en este caso de la administración que discrepa de las necesidades y sobre todo de los expertos y de los científicos y cuál es la razón de hacer firmar el denominado consentimiento informado a los que siendo menores de sesenta años tienen que someterse a la segunda dosis de vacunación

y repetir la pauta y opten por repetir

astrazeneca espero que nos sean claros en lo que el consejo interterritorial manifiesta en lo que ustedes hablan y que nos lo trasladen aquí de una manera

discrepan de las decisiones de los expertos y de las agencias
europeas y de las agencias mundiales eskerrik asko barrio jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

solo para aquellas personas menores de sesenta años pertenecientes a colectivos esenciales que en su día recibieron la primera dosis de astrazeneca y que ahora la rechazan para optar a una segunda dosis de astrazeneca

el acuerdo establece la segunda dosis es pfizer y eso sí que lo sabemos todos

no la indicación es clara segunda dosis pfizer por su parte

que quienes quisieran seguir esa indicación excepcionalmente esto es no seguir esa indicación excepcionalmente

pero que para ello previamente sí debían de firmar un documento dando su consentimiento pero no nos equivocamos la indicación es clara pfizer como segunda dosis y excepcionalmente quien no lo quiera puede optar
a una dosis de astrazeneca eskerrik asko

gracias presidenta pues por eso le pregunto y por qué es decir es que con el tema de la segunda dosis de la vacunación de astrazeneca

atiende atónita y preocupada por lo que pasa señora consejera es un tema de salud pública no de salud privada es decir el departamento de salud osakidetza el labi el consejo interterritorial

atenerse a no sé qué consecuencias y firmar no sé qué documentos explíquenos por favor lo que pasa en el consejo interterritorial del sistema nacional de salud no me hable de otras comunidades autónomas hábleme de usted dígame qué le dice usted al ministerio cuando le dicen

usted no solo va representando a eusko jaurlaritza usted va representando a todos los ciudadanos y además

sean vacunadas la segunda dosis se preguntan por qué cuál es la razón de verdad

son los precios es la ineficacia negociadora de las administraciones nos tienen que decir el porqué de todo esto cómo hemos llegado aquí porque con la

con el suministro en relación con las edades en relación en este momento con la segunda dosis

con lo que es lo procedente en la vacunación es decir seguir la pauta de la misma vacuna es decir qué expertos avalan qué documentos

vacunado con astrazeneca de verdad porque los expertos del otro lado sí que los conocemos y son amplios

el consentimiento debería ser además al revés el que se vacune con pfizer debería conocer la ficha técnica de su primera vacuna

por otro lado se critica el ensayo además del cóctel este por ser una decisión política

lo han decidido los políticos usted conocerá las claves y por favor le pregunto y le digo le pido

porque hay confusión en la sociedad y en la ciudadanía eskerrik asko barrio jauna

escucharle a usted es como escuchar la réplica de algún otro consejero casualmente de su partido que dice lo mismo pero no da ninguna respuesta

tienen que ser criterios científicos y técnicos y esos son los que han determinado que la segunda sea pfizer le invito primero a que lea el informe de la ema en detalle y todas las conclusiones segundo

la composición de la comisión de salud pública donde están representadas aquellas personas expertas de todas las comunidades sino todas las sociedades científicas y las academias y son esas esas que son expertas

lo de la oms han hecho la propuesta y la indicación de que la segunda dosis sea pfizer no me mire a mí porque no ha sido una decisión política y no quiera meter ahí el discurso político la decisión ha sido

y como le he dicho ya sabe quiénes componen esa comisión y nosotros lo que hemos hecho ha sido como hemos hecho siempre mantener un criterio

las decisiones de ese conjunto de expertos y expertas científicos a quienes se les ha encomienda y además hacerlo coordinadamente como decisión del consejo interterritorial por qué porque entendemos que en algo tan trascendente como esto

claros y consensuados y eso es lo que estamos haciendo y lo venimos haciendo

para todas las comunidades y una estrategia que se basa vuelvo a decírselo y se ha venido basando en todo momento en los criterios

decisiones adoptadas en el seno de la comisión de salud pública donde no estamos los políticos ni las políticas del consejo interterritorial lo que se trasladó fue la consulta al comité de bioética

y quien establece que se solicite ese consentimiento informado a quienes no quieren seguir la pauta establecida por la comisión de salud pública es el comité de bioética

porque es no continuar con la pauta establecida con criterios científicos y técnicos señor barrio eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

reclama respuestas aunque no solo creo que sean las muertes eta horri buruz

una tragedia tenía nombre y apellidos el día quince de mayo

y perdió su vida buscando sus sueños cuando trataba de cruzar el río bidasoa

pierde la vida precisamente tratando de mejorarla todos somos responsables de esta tragedia los gobiernos las asociaciones y la sociedad en general

mejorar y reorganizar las políticas migratorias y la atención humanitaria más allá de las fronteras vascas

supone un fracaso colectivo porque esto no es un problema individual de euskadi ni de españa sino que es un problema global

y trabajamos desde la cooperación institucional y social con lealtad

no determine el lugar donde pueden morir mantenemos un compromiso ético

y esta obligación moral nos ha llevado también a ser pioneros en el impulso y en la aprobación del pacto social vasco

interinstitucional y social que nos ha permitido trabajar conjuntamente en una respuesta a las necesidades que nos plantea la llegada de inmigrantes en tránsito

con las instituciones con los partidos políticos y con la sociedad civil en el pacto social por la inmigración en euskadi
y seguimos trabajando en esa línea señora kortajarena eskerrik asko

estaltzea esto está pasando y lo tenemos que hacer visible tenemos que decir

irún y hendaia que estas están construidas contra nuestra voluntad y que en ellas se producen devoluciones en caliente y que se incumple el derecho internacional

esan behar dugu ozenki tenemos que decir que exigimos un cambio radical

migratoria española francesa y europea y que es urgente que es urgente que se garanticen

señora kortajarena en esta cuestión tenemos pocas discrepancias

tienen una atención como sabe hemos sido transparentes hemos dado toda la información el dispositivo habitual de hilanderas gestionado por cruz roja atiende cada día más de cincuenta personas como media

contamos con una mesa interinstitucional que está liderada por mi departamento para responder a los diferentes escenarios que se están produciendo y que se puedan dar en el futuro no esta mesa ya en su momento elaboró un plan de contingencias que tuvimos que activarlo en marzo ya que en solo mes y medio tuvimos que dar respuesta a más de un millar de personas porque también

que no sabemos como ustedes dicen dar respuesta creo que tenemos preparado el sistema para dar una respuesta humana sostenible y además

la atención humanitaria está por tanto organizada y está asegurada

cuidar el trabajo interinstitucional es trabajar

y creemos que tenemos que seguir avanzando en esa política que no solamente se va a solucionar en españa ni en euskadi
sino que tiene que ser europea eskerrik asko eskerrik asko sailburu andrea